buenas tardes gracias presidenta con esta moción

de una ponencia parlamentaria para impulsar los cambios que sean necesarios en la ley

de lograr la modernización la despolitización y la profesionalización del tribunal vasco de cuentas públicas cuya credibilidad y seguramente esto sea lo más importante se ha debilitado gravemente con el paso de los años y especialmente en los últimos años y especialmente

proponemos una ponencia en lugar de una propuesta cerrada para que los distintos grupos puedan realizar libremente sus aportaciones y

excesivamente cerrada o concreta y porque es cierto que existen diferentes medidas que podrían plantearse para lograr los objetivos que pretendemos que son como digo la modernización la despolitización y la profesionalización del tribunal vasco de cuentas públicas durante el pasado periodo de sesiones realizamos una pregunta oral al gobierno vasco y más adelante

interpelación a partir de la cual decidimos registrar esta moción en aquellas iniciativas preguntábamos al gobierno si consideraba que el tribunal padece de politización y en el caso de que así lo considerase qué medidas consideraba el gobierno

el trabajo que le corresponde y cumpla mejor las funciones para las que existe de hecho objetivo de upyd que el tribunal vasco de cuentas públicas funcione mejor que como ha venido funcionando en los últimos tiempos y que el tribunal vasco de cuentas públicas cumpla mejor

bere eginkizunak hobeto betetzea en sus respuestas el

insistió en algunas cuestiones eta hurrengoa esan zuen

bere ordezkaritzapean egiten ditu bere lan guztiak eta gobernuak ezin du ezer egin y efectivamente tenía razón en estas cuestiones que planteaba el señor consejero además de explicar sucintamente el modo de funcionamiento del tribunal cómo se eligen sus miembros las funciones que tiene

que no depende del gobierno sino de este parlamento añadió alguna cosa más que nosotros no compartimos en concreto negó que hubiera ningún tipo de problema que corregir y que padeciera la politización que nosotros denunciamos y que a la vista está de toda la ciudadanía en todo caso esto es cosa de este parlamento de ahí que propongamos esta moción y la ponencia

los diferentes grupos puedan plantear ahí sus iniciativas y podamos debatir sobre la cuestión y podamos pactar entre todos de manera abierta esas medidas que podrían implementarse los problemas internos del tribunal actual y su politización son un hecho más que evidente que solo lo pueden negar

o quienes pretendan sostener un sistema que les beneficia o que en un momento determinado pudiera beneficiarles las broncas enredos y polémicas vividas en el seno del tribunal con el motivo del informe que debiera elaborar

un problema que viene de antiguo nadie puede negar esta politización en nuestra opinión y se trata por lo tanto de acabar

y cumpla sus funciones que tiene encomendadas tal como le dije al consejero no puede ser que los miembros del tribunal vasco de cuentas públicas respondan

a los intereses de los partidos políticos o grupos parlamentarios que los eligieron esto no puede ser y ha venido ocurriendo en el pasado este hecho

en el caso epsilon e hiriko que los medios de comunicación

entre unos y otros no citaban a los distintos miembros del tribunal vasco de cuentas públicas como consejeros del tribunal sino directamente como

partidos políticos y en la mayoría de los casos incluso como los propios partidos políticos insertados en el tribunal y así se señalaba que

o el partido socialista o el partido nacionalista vasco defendía tal cosa en el seno del tribunal vasco de cuentas públicas porque efectivamente se entiende

parlamentarios tienen como último objetivo defender

los intereses políticos de los diferentes grupos parlamentarios y en todo caso ya digo ha ocurrido y puede seguir ocurriendo en el futuro y esto

del tribunal ya es un hecho que ha perdido la credibilidad ya es un hecho para muchos ciudadanos el tribunal vasco de cuentas públicas no tiene credibilidad

porque lo conocemos todos y porque además ha habido más casos en el pasado ha habido más casos que nadie puede negar ya el señor azkuna

hace algunos años en concreto en el año dos mil nueve acuso al tribunal de no ser independiente y de actuar con perjuicios partidistas en el caso en concreto el regidor bilbaíno acusó al organismo fiscalizador de estar politizado acusó de falta de imparcialidad a sus integrantes y afirmó

yo ya no me fío porque no tiene un espíritu independiente ya esto se decía en el año dos mil nueve hay más casos concretos por ejemplo el informe elaborado deprisa y corriendo en dos mil nueve referente a la compra de dólares por el museo guggenheim antes de la elección inminente de los nuevos miembros o el informe sobre cie automotiv un consorcio apoyado

en manos del partido nacionalista vasco o el informe elaborado sobre lanbide durante el mandato socialista

su falta de credibilidad ya es un hecho no creo que haya ni siquiera que demostrarla está ya encima de la mesa no tiene credibilidad y por lo tanto hay que impulsar reformas para que recupere la credibilidad pérdida y ahora se trata ya digo de impulsar las reformas legales pertinente para devolverle esa credibilidad introducir

modernizarlo profesionalizarlo y despolitizarlo una cosa es que haya debate en el seno del tribunal otra cosa muy distinta es que se convierta

partidistas una cosa es que haya distintas opiniones o versiones o puntos de vista otra cosa es que de manera tan evidente las opiniones de algunos miembros o de todos

de los partidos políticos o de los grupos parlamentarios que los eligieron esto

y estos hechos son en nuestra opinión irrefutables todos ellos aunque especialmente uno que el tribunal vasco de cuentas públicas ya está bajo sospecha

y estudiar las distintas opciones para modificar la ley y volver a convertir al tribunal en un órgano útil de fiscalización al menos mientras siga existiendo que es otra cosa que también se pone en cuestión

pero lo cierto es que a día de hoy el tribunal vasco de cuentas públicas existe bien

existiendo en nuestra comunidad se trata de profesionalizarlo de modernizarlo y se trata de que funcione correctamente las funciones que tiene este tribunal son extraordinariamente importantes y por lo tanto pensamos que algo debe hacerse pienso que esta es una moción que pueda ser

por los distintos grupos hemos comprobado que no hay ningún tipo de enmienda con lo cual puede ocurrir que haya grupos que estén a favor de esta moción y voten a favor de ella y luego ya en la ponencia cada cual presente sus iniciativas y puede haber

de que haya grupos que voten en contra porque consideren que no hay nada que cambiar decir a día de hoy que no hay nada que cambiar

interno del tribunal vasco de cuentas públicas sinceramente y humildemente creo que es vivir de espaldas a la realidad de los hechos nada más y gracias

señorías señor lehendakari señora uriarte

señor maneiro mi grupo va a apoyar su moción es importante desde nuestro punto de vista

como la del tribunal vasco de cuentas públicas desde hace veintiséis años y que necesita mejoras y eso es indudable el mundo de la fiscalización de las cuentas públicas ha avanzado de una manera impresionante

factible que es interesante adaptarlas a nuestro ordenamiento jurídico

además mi grupo ya estaba trabajando en ello ya está trabajando en ello y tenemos propuestas que realizar

y lo haremos encantados en la ponencia si esta se aprueba la ley del tribunal vasco de cuentas públicas es necesario

modernas nuevas técnicas de fiscalización de cuentas públicas

más transparencia hay que pensar y que sea más eficaz más rápido

y desde luego que podemos trabajar sin duda

al principio la ley del tribunal vasco de cuentas públicas vino de un proyecto de ley del gobierno

el tribunal vasco de cuentas públicas es un órgano que depende del parlamento vasco y seremos nosotros los que pensemos cómo

en la casa de la ley desde luego nosotros mismos tendríamos que hacerlo o sea que tanto en este tipo de iniciativas a través de una ponencia como en la presentación de una proposición de ley está claro que es donde tiene que funcionar el cambio tan necesario

para esta ley del tribunal vasco de cuentas públicas además nosotros ya entendemos que debería de haber dos principios para la modificación de una ley del tribunal vasco de cuentas públicas

y el de la legitimidad de su funcionamiento en relación con la legitimidad de origen el nombramiento parlamentario es tan válido como cualquier otro

pero exige una búsqueda de refuerzo de mecanismos de independencia y en eso coincidimos en el caso vasco se exige mayoría absoluta en la elección en otros parlamentos se pide

deberían primar su currículum profesional no deberían ser elegibles personas

dentro de los trabajos de una ponencia de una reforma legislativa el miembro del tribunal vasco de cuentas públicas no podrá ser nombrado después de su cese

la ley debería recoger expresamente que el parlamento y los ciudadanos tienen derecho a conocer todas las decisiones tomadas por los miembros del tribunal vasco de cuentas públicas significa como mínimo que las actas de los plenos se publicarán en la sede electrónica del tribunal efectivamente como ya han acordado la autoridad fiscal independiente o el banco central europeo por ejemplo la ley debería incluir un apartado sobre incompatibilidades del personal eventual

similar al régimen de los miembros nombrados parlamentariamente la ley debería incluir

reincorporarse a su puesto cuando hayan estado desempeñando cargos públicos o hayan sido nombrados personal eventual de otra entidad del sector

hay elementos para analizar muy importantes hablábamos de otro principio la legitimidad de funcionamiento

deben ser los señalados por las normas internacionales de fiscalización del sector público y adoptadas por los tribunales de cuentas el ente fiscalizado tiene derecho a conocer las normas de fiscalización que se le van a aplicar por lo que estas eran públicas eso hay que trasladarlo seguramente a la ley el tribunal pondrá a disposición del parlamento y de los órganos de justicia cualquier documento o soporte del informe correspondiente eso también

efectivamente en esta ley en esta ley importante en esta ley del ochenta y ocho

modificada también por una ley de dos mil doce en relación con las entidades participadas o financiadas mayoritariamente por el sector público de la comunidad autónoma de euskadi pues hay trabajo que realizar

atendiendo también a cuestiones ya puntuales de la ley podríamos hablar y lo haremos en la ponencia que seguro se va a aprobar

modificaciones de la ley del tribunal vasco de cuentas públicas esa ley uno barra ochenta y ocho

en lo referido a la contabilidad de los procesos electorales o a la fiscalización de las asociaciones y fundaciones vinculadas a los partidos políticos en relación con sus sedes sociales

la accesibilidad que los ciudadanos puedan acceder a la totalidad de los informes emitidos por el tribunal vasco de cuentas públicas

a través de su sede electrónica en la institución financiera o también cuestiones que tienen que ver con la función fiscalizadora de ese ámbito

la función deberá ser financiera sí pero también operativa y de cumplimiento y que eso se sepa y que eso se diga y que eso se haga

su informe en el primer semestre del ejercicio siguiente a la fecha de presentación de la liquidación de los presupuestos cuestión muy importante que eso no se cumple hasta la fecha hay que hablar mucho de eso o en relación desde luego con otros ámbitos con otras cuestiones como la composición

por ejemplo no puedan ser elegidos miembros del tribunal vasco de cuentas públicas como comentaba antes quienes

de gestión inspección o intervención en fondos o caudales públicos también por ejemplo

una declaración de no incompatibilidad son elementos que se pueden regular y que las leyes cada vez los regulan de una manera más estricta y clara en relación

esos tribunales y esos órganos que buscan esa independencia

de cómo vayan los miembros del tribunal a comparecer a las comisiones parlamentarias o de otras instituciones donde sean llamados de cómo sean

o de más miembros del tribunal vasco de cuentas públicas o del tribunal de cuentas

mucho terreno de juego para mejorar el funcionamiento del tribunal vasco de cuentas públicas el señor maneiro nos da una oportunidad de trabajar sobre ello nosotros no la vamos a rechazar vamos a entender

que es interesante y que podemos aportar tenemos trabajo que hacer y tenemos desde luego propuestas

presidenta señorías el señor maneiro nos propone

una ponencia y lo basa en tres criterios en lo que se refiere a la iniciativa porque habrá que recordar que esto viene de una

que el propio señor maneiro ha venido haciendo en los últimos meses y que de alguna forma por simplificarlo mucho

resumir en que él está absolutamente convencido de la falta de profesionalidad de la falta de ética y de la falta de muchos valores que se debieran presuponer

esto lo ha venido sosteniendo en sus diferentes intervenciones hoy nos presenta una cosa más escueta aunque vuelve a incidir también en estos aspectos nos dice que se haga una ponencia para profundizar en la profesionalización para profundizar en la despolitización

profundizar en la modernización bien como ha terminado su intervención diciendo que esta era una

empezando por la humildad le recomendaría que sobre la modernización primero supiera que está haciendo ya el propio tribunal porque es cierto que el país vasco cuenta con el tribunal vasco de cuentas que tiene

en muchos de los aspectos del funcionamiento y de la capacidad fiscalizadora también incluso del volumen de trabajo y que por lo tanto sabiendo que la modernización es algo que tiene que ser una actividad constante sin embargo

ha habido la última convención o el último encuentro

en los que efectivamente se avanza sobre ideas de modernización sobre incorporación de técnicas de fiscalización sobre nuevas formas de trabajar

de quienes realmente están en ello y que saben de lo que están hablando y no estaría mal si el tribunal vasco de cuentas lo considera oportuno pudiera hacer una comparecencia y pudiera plantear elementos criterios requisitos de modernización que puedan ser

el tribunal vasco de cuentas es una institución pública que nace de las competencias

y que se crea por ley de este parlamento y que además está también compuesto por la decisión soberana mayoritaria de este parlamento por lo tanto yo creo que

se trabajara en el ámbito que es razonable hacerlo y no en un ámbito tan abierto que de entrada no se propone absolutamente nada

concurso o concurrencia de ideas o concurso o concurrencia de ocurrencias en fin no creo que este sea el camino pero quizás esta sería la parte más constructiva de lo que ha podido plantear en su propuesta los otros dos aspectos que ha querido incorporar el de la despolitización y el de la profesionalización yo diría que suenan a provocación suenan a falta de respeto

a este parlamento y al propio tribunal vasco de cuentas y desde luego nosotros por ahí no vamos a pasar se supone que cuando el

porque si fuera profesional no tendría porque profesionalizarse

sobre cuál es la capacitación de ese tribunal y eso me parece que es una falta de respeto

pero impropia para ser de recibo en un parlamento por lo menos por el grupo socialista

una despolitización con lo cual ya hace un juicio y una sentencia de que hay una politización es decir que los miembros del tribunal vasco de cuentas

a disposición de quienes les nombran a disposición de los partidos que los proponen

criterio propio de ética propia de capacidad de resolver y de honestidad además para resolver de acuerdo a las normas porque anteponen la política a los procedimientos que tienen que seguir para cumplir con las funciones que le ha encomendado este parlamento

una provocación y una falta de respeto y de consideración francamente notable que vuelvo a repetir que es propio de usted se ha convertido en una especie de esencia de los valores parece que solo lo que sale de su boca es correcto y está bien y por lo tanto se permite repartir credenciales de honestidad y de rigor

como le he dicho anteriormente efectivamente esto es una provocación

a este parlamento y a los miembros del tribunal vasco de cuentas pues tampoco va a ser de recibo por parte de nuestro grupo

está haciendo mire usted funciona con muchos prejuicios y por eso quiere convertir en política lo que son sus sospechas y sus especulaciones que nacen de sus prejuicios sus sospechas y sus especulaciones esto yo lo definiría como la gran antipolítica es decir usted probablemente le voy a suponer hasta que usted puede tener buena intención pero tras esa buena intención de querer velar por la ética y la honestidad de todo está permanentemente lanzando sospechas y está permanentemente lanzando especulaciones

como para que usted lo haga de esta forma y además utilizando esta cámara y por eso ya le digo

esta propuesta de ponencia que usted nos está planteando mire yo puedo coincidir con quien de buena voluntad perciba que

no por fiscalizar que tiene una gran producción de fiscalización sino por ser noticia solo por aquello que es su función

hacer fiscalizaciones y por lo tanto llevar las conclusiones del pleno del tribunal vasco de cuentas a esta cámara

las sociedades o instituciones que hayan sido auditadas y al conjunto de la sociedad es cierto que a veces algunos protagonismos particulares y usted sabe muy bien cuáles son algunas ganas de jugar a ser estrellas por razones extras a lo que tienen que ser los informes del parlamento

a algunas actuaciones pero a mí eso no me escandaliza demasiado

las instituciones mediadoras o fiscalizadoras

opinión propia o no puedan tener tendencia política o tendencia social o de lo que sea hasta que no hagamos ese tipo de planteamientos de carácter frío para poder hacer estas funciones

para equivocarse y para rectificar yo creo que alguien se ha equivocado en el tribunal vasco de cuentas

y efectivamente ha habido alguna controversia en el tribunal vasco de cuentas pero es una controversia que está ajena a lo que es su papel fiscalizador su papel fiscalizador lo ha hecho lo ha cumplido y ha resuelto y ha hecho un informe

y alguien que tendría que defender ese trabajo colectivo no lo ha hecho y cuando no lo ha hecho

particular de alguien es donde hay que buscar la corrección pero esto ni invalida ni mancha lo que es la función del tribunal vasco de cuentas por lo tanto yo le invito a que recupere el respeto hacia el tribunal vasco de cuentas a que recupere el respeto

y el respeto político de una institución que ha sido creada por este parlamento y compuesta por este parlamento efectivamente todas las leyes que se hacen en este parlamento podrían entrar una a una

todas pueden ser modernizadas y todas pueden ser mejoradas pero cuando se legisla se legisla con una vocación se legisla para un tiempo y se intenta que cumpla una función y el tribunal vasco de cuentas está cumpliendo esa función si en algo usted

de decir que no cumple con su función que no fiscaliza que lo hace mal que no contempla las

funciones que le tiene asignadas la ley denúncielo pero denúncielo en concreto y si no

que esté en una posición mucho más prudente sus sospechas y sus especulaciones no van a hacer antipolítica en este parlamento con el concurso del partido socialista muchas gracias

el nombramiento de los representantes de la cámara en el tribunal de cuentas requiere una mayoría cualificada tiene que haber mayoría absoluta

después de veintiséis años de funcionamiento correcto resulta que la actuación como

portavoz del grupo socialista el señor prieto que la actuación personalista

con ansias de notoriedad ha puesto en solfa el tribunal como usted señor maneiro

en su interpelación esto es un hecho insólito y durante los veintiséis años de vida del tribunal sus miembros se han elegido del mismo modo

y quién nombra a esos miembros cuya legitimidad nuestro grupo parlamentario defiende como ya he dicho y en ningún caso cuestiona sino que

actual y las preguntas que debemos formularnos son con qué interés

es su notoriedad personal la que le lleva a actuar de este modo tal vez servir a algún interés superior puede tener

que el gobierno español propone adoptar al respecto lo único politizado señor maneiro en este momento del tribunal vasco de cuentas públicas

es el señor churiaque en cuanto a la actualización de la ley legearen eguneratzeari buruz pinedo andrea beharrezkoa dela

gure ustez momentu hau ez da momentu aproposa estamos viviendo un momento de transición dada la multitud de modificaciones que el estado

y que tienen incidencia en el desarrollo del tribunal vasco de cuentas públicas el proyecto de reforma de la administración pública afecta al tribunal pero aun no se puede delimitar en cuánto se anticipa que están preparando una nueva ley de régimen jurídico de las administraciones públicas separada de la de procedimiento administrativo la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local

pero ha dejado muchas cuestiones abiertas a desarrollo posterior y otras que modifican

y el texto refundido de la ley de las haciendas locales que necesitan de aclaración o desarrollo posterior la manifiesta voluntad

le ha llevado a proponer en reiteradas ocasiones y a cuestionar la pertinencia de organismos autonómicos que considera

el tribunal vasco de cuentas usted dice que este debate debe ponerse también encima de la mesa y a usted evidentemente como medida recentralizadora le gustará con este animo rencentralizador

que ellos llaman nacional nosotros le llamaríamos en todo caso estatal de reformas que el gobierno español propuso a la unión europea

o la reversión de algunas competencias ese documento ha sido analizado en profundidad por el gobierno vasco y recientemente el consejo de gobierno ha aprobado una propuesta de acuerdo en relación a las medidas impulsadas por la comisión para la reforma de las administraciones públicas es este documento que

nuestro grupo parlamentario está totalmente de acuerdo con la respuesta que en relación a la supresión del tribunal vasco de cuentas públicas da el gobierno vasco

en el planteamiento del gobierno español decían no se cuestiona la competencia de las comunidades autónomas para crear los órganos de control externo plantea no obstante que sean suprimidas y sus funciones atribuidas

el documento remitido por el gobierno vasco concluye en este apartado esta es la conclusión del gobierno vasco que nuestro grupo parlamentario comparte y apoya dice la medida de su presión del tribunal vasco de cuentas públicas herri kontuen euskal epaitegia

y no se haya suficientemente justificada por los argumentos esgrimidos por la administración general del estado nosotros con esto por nuestra parte daríamos el debate de la posible recentralización en este tema por cerrado

insistimos en un escenario de tanto posible cambio normativo consideramos que es mejor esperar y reflexionar en un contexto normativo más

a nuestro juicio lo que la prudencia aconseja guzti honegatik maneiro jauna zure legebiltzar taldeak edo zuk zeuk aurkeztutako mozioaren

sí gracias presidenta en primer lugar agradecer a los grupos que han anunciado su voto favorable a esta

que ha aportado al debate de hoy planteando propuestas concretas muchas de ellas ciertamente

podrían ponerse en marcha si una mayoría de grupos quisiera tal como proponemos nosotros la modernización la profesionalización y la despolitización del tribunal vasco de cuentas públicas pero efectivamente la mayoría otra vez del partido nacionalista vasco

impedir que nada cambie en relación al tribunal vasco de cuentas públicas lo cierto es que hay tantas cosas por hacer ya digo que el señor barrio ha apuntado algunas que ciertamente parece mentira que haya quien vote en contra de esta moción parece mentira no es que vivan

sino que se puede afirmar ya en muchos casos que hay distintos partidos políticos que viven en contra de la sociedad para defender sus propios

considera que plantear una ponencia donde los diferentes grupos planteen sus propuestas para impulsar estos cambios

un insulto y una provocación y me pide humildad bueno la moción planteada no tiene otro objetivo que es que está planteado

lo hacemos con esa voluntad y la humildad consiste en plantear esta moción en forma de ponencia abierta para que entre todos fuéramos capaces de

de los diferentes grupos plantea usted que el tribunal vasco de cuentas públicas pudiera comparecer qué mejor marco que la propia ponencia donde el tribunal vasco de cuentas públicas pudiera comparecer y efectivamente pudiera señalar cuáles podrían ser esas medidas modernizadoras que son tan

me pregunta usted si considero que los miembros del tribunal vasco de cuentas públicas son marionetas yo no he dicho

marionetas lo que sí he dicho y a la vista de todos está es que los propios miembros del tribunal vasco de cuentas públicas se han acusado entre ellos de defender determinados intereses políticos y a la vista está y todo el mundo lo ha visto menos el partido nacionalista vasco y el partido socialista de euskadi habla el señor txarli prieto de antipolítica y considera esta iniciativa una provocación y un insulto

la antipolítica no es tratar de cambiar las cosas para mejorarlas no es denunciar todos estos hechos que estamos denunciando la antipolítica es todo lo que ustedes han venido realizando en los últimos años

es saquear las cajas de ahorros como ustedes y el partido popular e izquierda unida y diferentes sindicatos y organizaciones empresariales han venido haciendo durante los últimos años a lo largo y ancho de españa saquear las cajas de ahorros llenar sus bolsillos eso por ejemplo es antipolítica la antipolítica es la corrupción prácticamente generalizada que ustedes han venido ejerciendo

el partido socialista el partido popular y otros partidos políticos eso es antipolítica y antipolítica es no mover un dedo para

intereses que es lo que ustedes han venido a hacer aquí hoy intentando impedir que se modernice el tribunal vasco de cuentas públicas para qué para seguir teniendo del tribunal vasco de cuentas públicas personas que defiendan sus propios intereses y que puedan tapar en un momento determinado sus propios chanchullos como ha venido

cosa parecida niega los hechos no hay ningún problema según ellos el tribunal vasco de cuentas públicas funciona perfectamente bien pero la culpa la tiene el señor

de politización bien pues tomemos las medidas necesarias para que no exista esa politización por parte de ninguno de los miembros de ninguno

esto es lo que nosotros por lo tanto proponemos no es ninguna sospecha de falta de profesionalización de politización de defensa de los intereses de determinados partidos políticos es un hecho que toda la ciudadanía en su conjunto

durante los últimos años es un hecho no son sospechas a los hechos me remito hay innumerables ejemplos y algunos de ellos los he citado en mi primera

gorospe pueden ustedes asegurar que ningún miembro del tribunal vasco de cuentas públicas se ha puesto en contacto con sus partidos políticos para corregir pulir o modificar informes me pueden confirmar que esto es así nunca ningún miembro del tribunal vasco de cuentas públicas antes de elaborar un determinado dictamen o informe ha llamado al partido socialista o al partido nacionalista vasco para preguntarle qué era lo que tenía que hacer sí verdad lo han hecho efectivamente porque muchos de ellos han estado defendiendo sus propios intereses para tapar sus propias vergüenzas en fin como decía hace poco y leía yo un artículo
de opinión no puede ser maneiro jauna amaitzen joan mesedez no puede ser que los fiscalizadores sean nombrados por los fiscalizados algo así

del rebaño de corderos que tienen enfrente es

funcione bien cuando los grupos parlamentarios eligen a sus miembros sin otro objetivo que la defensa de sus propios intereses partidarios en esas negociaciones presupuestarias nunca se habla del perfil técnico de sus miembros sino lo que ustedes pactan es cuántos corresponde a cada uno y en tantas ocasiones se ha hecho cosa parecida a lo largo y ancho de españa en los órganos reguladores

lo contaminan todo ustedes lo contaminan todo maneiro jauna amaitzen joan saquen sus manos por lo tanto

y en fin modernícense también ustedes maneiro jauna eskerrik asko

una ley puede ser mejorada y esta sin duda lo puede ser que empezar ahora

en unas discusiones un poco estériles para la función que estamos tratando

nosotros valoramos y lo hemos hecho siempre valoramos la trayectoria del tribunal vasco de cuentas públicas hasta el día de hoy y a partir de hoy también

con modernización con profesionalización con adecuación a nuevos tiempos porque efectivamente hay nuevos tiempos en relación con la fiscalización de los tribunales de

que podemos mejorar por eso nosotros entendemos que necesitamos reformas

con toda la naturalidad del mundo porque es un órgano dependiente del parlamento vasco

que hacer aquí la verdad es que

el modo de debate que quiera para rechazar las propuestas de los demás yo

de la propuesta que ha hecho el señor maneiro pues he hablado de principios

legitimidad de origen he hablado del principio de legitimidad de funcionamiento he hablado de modificaciones puntuales en relación

con la composición con la organización con los plenos con el trabajo con la publicidad

a repartir el partido nacionalista vasco ya ha empezado a poner nombres y apellidos de los causantes claro como que ellos

con otras instituciones y de otros presidentes del tribunal en relación con el ejercicio de su trabajo

el problema es la animadversación que tiene el partido nacionalista vasco

por su capacidad por su competencia profesional por su preparación académica

además el partido nacionalista vasco no puede soportar

de cuentas públicas lo presida alguien que no puede dar cuenta todos los meses en la asamblea del pnv

ese es el problema y ustedes lo saben

nunca jamás un miembro del tribunal vasco de cuentas públicas nombrado a instancias de la candidatura

partido popular ha pedido ningún tipo de instrucción ni nosotros se la hemos dado nunca jamás

eludido el debate de fondo el debate de la necesidad de modernizar el país

seguirá incidiendo en la animadversión es que la mala suerte que tiene que el presidente del tribunal ahora en este caso no puede dar cuenta ante los órganos del partido pero bueno ímpetu centralizador del estado

usted no me ha oído a mí lo que he dicho yo en relación con la necesidad de la reforma yo he hablado

suprimir el tribunal vasco de cuentas públicas yo he hablado de que tiene que formar parte del tribunal de cuentas del reino del estado yo no he dicho eso al revés usted no me ha oído entonces

yo he hablado de los mecanismos que queremos para reforzar la independencia la profesionalidad la modernización del tribunal vasco de cuentas publicas y eso he hablado

la iniciativa del señor maneiro porque era un buen canal y era un buen sitio para canalizar esas propuestas e ideas habrá otras desde luego en este parlamento vuelvo a decir el tribunal de cuentas es órgano dependiente de este parlamento y podremos

cuando alguien dice las cosas el presidente del tribunal de cuentas o cualquier otra persona pues

y habla en función de esa independencia parece que hay que criticarle pero mire esta mañana se nos hacían alusiones a la verdad y

a los judíos según el evangelio de san juan la verdad os hará libres y el que habla y el que dice y el que se expresa con claridad y dice la verdad
pues también él es libre muchas gracias eskerrik asko barrio jauna

gracias presidenta estamos en el turno de más de lo mismo y por lo tanto yo también le voy a dar un poquito más de lo mismo mire es muy habitual en usted señor maneiro que cuando usted es incapaz de proponer algo concreto

denunciar algo concreto cuando es incapaz de llevar al sitio donde tenga que llevar aquellas cosas que se escapen a la ética o al funcionamiento de la ley cuando es incapaz de todo eso pero quiere destacar

usted a lo que se dedica es a hacer generalizaciones a generalizar la corrupción a generalizar los saqueos

las maniobras las manipulaciones a generalizar las contaminaciones y mire eso es profundamente antidemocrático y usted debería de pensar en ello

estoy seguro de que no es su voluntad que no es intención pero termina siendo su ejecución

en muchas ocasiones un comportamiento profundamente antidemocrático que por cierto lo suelen hacer aquellos que

que es poner bajo sospecha a colectivos enteros que es estigmatizar a colectivos enteros que es poner en el disparadero a colectivos enteros

a todo un partido plantea que vive en la corrupción generalizada que vive en el saqueo generalizado o que vive en la manipulación y en la contaminación generalizada usted está haciendo una manifestación profundamente reaccionaria profundamente antidemocrática y

a rectificar tiene tiempo a aprender y tiene tiempo a corregirse

ni de los saqueos ni de las corrupciones ni de las manipulaciones cuando tenga algo concreto llévelo donde lo tiene que llevar y procure que se haga justicia y no demagogia como hace permanentemente aquí usted está acostumbrado

tan fácil como sucia que es venir aquí a soltar estopa por todos los lados a generalizar sus sospechas y sus especulaciones

por la ausencia de un proyecto político por la falta de representatividad para defender algo con seriedad por su incapacidad para influir políticamente de verdad en las decisiones políticas de la sociedad yesa frustración que tiene usted

no la pague permanentemente con este parlamento no utilice tan mal los instrumentos de la democracia no utilice tan mal los instrumentos de la política no utilice tan mal una cámara de representación del conjunto de la ciudadanía solamente aquí a tratar de sacar planteamientos propuestas ideas

soflamas políticas que no tienen absolutamente nada que ver con la realidad usted viene hoy aquí a plantear una ponencia

de qué se podría tratar en esa ponencia no ha sido capaz de concretar absolutamente nada ni en la modernización ni en ninguna de las demás cosas usted viene hoy aquí a plantear una ponencia

nada que sirva para orientar cómo o para qué habría que hacer esa ponencia usted viene solamente a lo de siempre a ver si gana un pequeño titular

de sacar la cabeza debajo del ala y como esto es lo único que sabe hacer y como ya está como se ve perfectamente detectado yo le animo a que no use más veces esta tribuna para hacer planteamientos

ni propondría el gobierno la ley de la administración pública vasca porque también está el tema movido

podrían realizar planteamientos sobre nuevos estatus que se quieren poner sobre la mesa ni habría una ponencia para estudiar

cómo realizar o revisar el autogobierno estaríamos

esperando que las aguas vuelvan a su cauce en el estado español y no podemos estar esperando a que el estado español haga sus deberes

hori egiteko hablaba usted del perfil técnico de los miembros del tribunal le he comentado

y un currículum que nosotros todos manejamos y además nombramiento por mayoría absoluta de esta cámara que no es broma

que tiene veinte años de antigüedad además las y los auditores jefes vinculados al consejero y a las consejeras mediante nombramiento también a quienes se les requiere también la misma antigüedad

equipos con un perfil técnico absolutamente claro y probado usted decía que yo había venido

quien ha adoptado medidas es a quien le corresponde el propio tribunal vasco de cuentas

el tribunal vasco de cuentas esta semana ha reprobado en una declaración institucional la actuación de churiaque es quien corresponde quien lo ha hecho nos preguntaba si nosotros podíamos afirmar

si a lo largo de la historia del tribunal vasco de cuentas públicas algún miembro

había recibido alguna orden de nuestro partido puede usted afirmar y asegurar todas las barbaridades que usted suele afirmar de manera

gratuita en este tribunal o con pedir disculpas después es suficiente y señor barrio en relación con este tema que usted ha venido aquí bravucón a afirmar yo le puedo asegurar que el presidente nombrado por el partido popular

si esta es la credibilidad de lo que nunca ha recibido órdenes

cruce de correos electrónicos agradeciéndose capotes

o sea que me hace mucha gracia que venga usted a decir esto como prueba y evidencia

como sea todo así impresionante la falta de credibilidad a la que usted se refiere afecta única y exclusivamente

vasco de cuentas públicas una responsabilidad personal e intransferible

es la única responsabilidad que hay y para terminar señor maneiro usted decía en su interpelación que en este país

está prácticamente todo bajo sospecha y que así llegará el populismo y el discurso de la antepolítica

es su estrategia señor maneiro y esta es la estrategia de upyd poner todo bajo sospecha usted señor maneiro usted es un claro representante del populismo recentralizador español
todo bajo sospecha y en esta estrategia nuestro grupo parlamentario no le va a seguir el juego eskerrik asko eskerrik asko gorospe

señora presidenta señorías podríamos llegar

aquí y ahora departamentos

administraciones públicas sanidad creando manteniendo o reclamando para sí redes de centros

ese despilfarro esa disfunción esa ineficiencia

que viene sosteniendo el departamento de desarrollo económico y competitividad en relación a los cinco centros

y náutico pesquera con un empecimiento

de mejor causa con un tesón que no se corresponde con los tiempos señorías en un momento en el que ya pasó en el año mil novecientos noventa y tres la ley de la escuela pública vasca y que puso a toda esta administración y a todo este parlamento

ordenar el sector de tal manera que aquellos centros que impartieran enseñanza

en un momento en el que no solamente la legislación del país del grande

del ámbito europeo está ordenada de tal manera que la formación profesional es competencia en prácticamente todas las administraciones de educación en aquellas enseñanzas que son conducentes a titulación y de empleo en aquellas

a certificados de empleabilidad unidades de competencia

en este momento señorías son los departamentos de educación y de empleo los competentes las cabeceras los titulares de aquella formación profesional sea en materia agraria

sea en materia sanitaria o en medios audiovisuales porque a fin de cuentas todo es educación es calidad es equidad es investigación es innovación

por tanto por qué estos cinco centros han de quedar desregularizados desordenados separados en otro lugar diferente al que pueda ser el departamento de educación en un caso y al departamento de empleo pues bien así estaban las cosas al fin que pudieron ser ordenadas tras las transferencias de las políticas activas de empleo en dos mil once recibidas por el anterior gobierno

lo que es todo un itinerario de desarrollo de un decreto que en esta administración viene a tardar ocho meses yendo las cosas bien así nos suele pasar

que realmente viene a ser este el tiempo medio lo que empezó su itinerario a primeros del dos mil doce concluyó en agosto del dos mil doce con un decreto

ciento cincuenta y ocho barra dos mil doce afirmando la integración de estas enseñanzas que primero fueron mendikoi y luego itsasmendikoi y más tarde englobadas en la fundación hazi en el departamento

las cosas fueron así de tal manera que el decreto de áreas del nuevo gobierno del gobierno vigente del

deja las cosas como estaban ese decreto de áreas

en marzo de dos mil trece con un decreto que pretende atribuir y revertir otra vez estas enseñanzas estas cinco escuelas

a la competencia del departamento de desarrollo económico y competitividad una cuestión ciertamente anacrónica una cuestión que desordena y una cuestión que no se compadece en lo absoluto

el departamento de educación y el departamento de empleo en estas enseñanzas esto es así y efectivamente

y competitividad comienza a negociar o comienza a tratar de ver cómo puede gestionar este asunto habida cuenta de que tanto todo el personal laboral tanto docente como no docente había sido traspasado a educación

y finalmente llegan a pensar que una orden conjunta podría solucionarlo y yo les pregunto señorías y pregunto al gobierno y esto para qué

por qué porque si pensamos bien señorías

ninguna razón para hacerlo y como no queremos pensar mal y como en los sucesivos debates este gobierno

ha venido sosteniendo que la ley diecisiete barra dos mil ocho era el obstáculo para hacer lo que el anterior gobierno hizo entonces yo creo que la derecha

una propuesta una proposición de ley del grupo socialista de modificación de la ley diecisiete barra dos mil ocho porque si el obstáculo está en dos artículos de esa ley y resulta por lo que hemos podido comprobar que casi toda la cámara

está buscando genuinamente el mejor anclaje para estas cinco escuelas pues lo mejor

en esos dos artículos somos enteramente dueños de hacerlo

la proposición de ley que traemos busca la intervención mínima

es modificable susceptible de modificación para su mejora y para su actualización en muchísimos capítulos pero buscamos la intervención mínima

que en aquellos artículos en los que deja la competencia cabecera en formación náutico pesquera

que es en el departamento mencionado allí se diga con toda claridad que esa competencia reside en educación y en formación para el empleo mientras que agricultura el departamento competente en agricultura

puede asesorar puede colaborar puede

no cada enseñanza sino si todo el proceso puede hacer muchísimas cosas y debe hacerlas lo que no debe hacer y lo que no puede hacer es ser titular competente cabecera de algo que es formación tanto sea formación educación como formación profesional hoy en día como ustedes saben señorías

y por lo tanto tiene que estar donde debe como toda la legislación vigente lo anuncia por eso traemos esta proposición de ley señorías para que cuando llegue

incluso con respecto a la nota de salida y para eso el debate pero hoy nos encontramos ciertamente con la proposición de ley y con

toma en consideración y con el acuerdo del gobierno que manifiesta su criterio favorable a la toma en consideración para el debate lo cual está muy bien y sin embargo nos deja un tanto estupefactos con el segundo párrafo la última parte

que la ley actualmente en vigor ya ofrece suficiente flexibilidad jurídica y material para organizar la formación profesional en el sector concernido

la ley diecisiete barra dos mil ocho no habría sido el obstáculo y si es el obstáculo parece que ha de ser nuestro empeño responsable

agradezco de antemano el apoyo que esta proposición de ley va a recibir esta tarde muchas gracias

lópez de ocariz andrea zurea da hitza señora presidenta si me lo permite

es coherente con el posicionamiento que ya expresamos en el debate que se suscitó en esta cámara en el mes de febrero donde se debatió una moción a propuesta del grupo popular y en la que instábamos al gobierno a que mantengan la formación agraria y náutico pesquera en el departamento de educación política lingüística

legales que sean necesarias dado que el gobierno no acierta a hacer esas modificaciones es la cámara la que nuevamente toma la iniciativa para que realmente

de que el departamento de educación política lingüística y cultura sea el responsable de la formación agraria y náutico pesquera nada más muchas gracias

y además ya hoy pues no tengo yo pues el cuerpo para discutir más

hemos votado favorablemente aunque nos ha sorprendido la presentación de la proposición de ley porque en cumplimiento de lo que se aprobó en febrero en este parlamento pues ya estaba el propio departamento negociando con los sindicatos la orden conjunta que la señora celaá

creemos que la ley quizás es excesiva pero es un documento más es posible

para cambiar una ley solo el decreto de área del gobierno

nos parece muy oportuno vamos a trabajar en ella en la comisión y nos veremos y discutiremos cuál es el formato que tiene la ley muchas gracias eskerrik asko

de bilbao lleno de visitantes llenos de turistas y en un momento dado los visitantes

otro lugar donde hacerlo hacen sus necesidades debajo de un kandisky o de cualquier otro cuadro pues eso es lo que está pasando hoy en día en otro patrimonio que tenemos un patrimonio paisajístico y un patrimonio medioambiental como es la única reserva de la biosfera

por el partido popular niega esta comarca la calidad óptima de las aguas que desembocan en la ría de mundaka en efecto en los presupuestos de dos mil diez no existe consignada financiación alguna para la terminación de la red de saneamiento

esto es urdaibai la famosa reserva de la biosfera la que debe preservarse

seguirá vertiendo sus aguas residuales a la ría incumpliendo así la normativa

urtean y el problema es que ni en el dos mil diez hubo partida pero tampoco lo hubo en el dos mil once pero tampoco en el dos mil doce

y en el dos mil quince qué hori da hain zuzen ere gure proposamenean

buenas tardes señorías nos encontramos nuevamente ante un tema recurrente en esta cámara

el señor damborenea presentaba una iniciativa en esta cámara pidiendo entre otras cosas el saneamiento

y en aquel momento ni ea ni el grupo

recuerdo como se llamaba se me ha olvidado ya después de tantos cambios votaron en contra necesario en el dos mil diez entonces ya hubo una unanimidad en esta cámara y sí entendieron necesario pero como se ha dicho aquí

reserva de la biosfera es el primer espacio protegido de la comunidad autónoma de euskadi el agua y los recursos

ya que fueron adoptados como criterio básico para delimitar el ámbito geográfico de la misma que se corresponde con la cuenca del oka ya en estas fechas en el año mil novecientos ochenta y cuatro el gobierno vasco elaboró

comarca la relevancia del recurso agua y de su gestión integral queda patente en los diferentes instrumentos de protección ordenación y gestión establecidos para urdaibai

insiste en el interés y el fin de proteger

las aguas la atmósfera el plan rector de uso y gestión incide en el mismo sentido todos los documentos de gestión fijan el interés en su uso racional de los recursos naturales y mantener los ciclos hidrogeológicos

establecer la necesidad de diseñar estrategias para la recuperación de las cuencas hidrográficas el mantenimiento de los ciclos hidrogeológicos naturales que aseguran la recarga de los acuíferos y la calidad de las aguas

funcionamiento de la red de drenaje además se especifica como deberes concretos recogida y tratamiento de las aguas residuales urbanas e industriales garantizando la calidad de las aguas fluviales y el establecimiento de un suministro de agua de calidad

nuevamente nos ponemos deberes posteriormente la declaración de zona sensible de la ría y su cuenca

sobre el tratamiento de aguas urbanas hace inviable el vertido

y a sus cuencas afluentes por lo tanto esto añade una mayor complejidad en todo el tratamiento de aguas residuales directiva europea que se traspone

que fija siete años como plazo para el cumplimiento de esta directiva europea nada se hace

otro incumplimiento mientras tanto qué hace el gobierno vasco alumbrar posibles proyectos estratégicos de museos de nombres de cifras pero para cosas

en cumplimiento de la normativa europea de las normas que se aprobaron en esta cámara

de la declaración de necesidades y de intenciones qué tenemos la realidad hoy es que el estado ecológico de la unidad hidrogeológica del oka según datos del propio gobierno es preocupante solo un siete coma cinco por ciento de cuenca presenta un estado ecológico

que se corresponde principalmente con las partes altas de los ríos un dieciséis coma treinta y siete por ciento es bueno el treinta y cuatro coma ocho por ciento es moderado un treinta y cuatro coma cincuenta y uno por ciento es deficiente

se concentra en torno a muxika y qué se ha hecho en estos treinta años desde que se redacto el primer

se han acometido obras sí las ha acometido el gobierno vasco no

las ha acometido el consorcio las ha acometido el gobierno central pero el gobierno vasco está

pues muy bajo de ejecución en las obras que le corresponden y qué tenemos tenemos obras inconexas en algunos casos y en otros casos sencillamente no están lo que hace inviable que las aguas residuales lleguen

a los ríos qué pasó en su momento cuando se empezó a hablar del saneamiento

todos los pozos sépticos de las casas si conocen la zona de urdaibai los caseríos las zonas

los pozos sépticos de tal manera que las aguas hoy van directamente a la ría

directamente a la ría y el señor portavoz de

es que van así las administraciones como decía comprometidas con estas inversiones el gobierno central las diputaciones la diputación foral el consorcio de aguas que es el que agrupa los ayuntamientos y el gobierno vasco

han invertido un total de ciento setenta y seis millónes de euros según los datos que la consejera dio en comisión son necesarias más

la realidad es muy tozuda y como el tiempo no pasa en balde nos encontramos ante un gravísimo problema por la dejación de la administración treinta años de incumplimiento treinta años de dejación y como pueden suponer las alarmas en esta zona están a punto

desde el grupo popular tenemos claro que estamos ante una situación limite y este

apuesta de gobierno para dar una solución urgente a un problema muy delicado en este momento y sí como vemos

el plan de implantación del euskera que se ha sacado trescientos cincuenta millónes pues entendemos que para esto también tendrá

y es la enmienda que nosotros presentamos y que hemos llegado a un acuerdo con el grupo nacionalistas vascos cambiando el plazo

que pedíamos un plazo de un mes y lo que hemos hecho es ampliarlo

lo que pedimos es que el parlamento vasco

en el que se recojan los puntos siguientes que elaboren un calendario que contemple las obras pendientes y necesarias para finalización

que se especifique en el calendario cada una de las actuaciones y aspectos necesarios para la ejecución de las obras plazos y presupuesto que afecta a cada una de ellas que se presenten las cantidades necesarias para la ejecución de estas obras en función de los plazos previstos que se presupuesten y que se elabore

de gestión viable cuando hablo de plan de gestión viable y lo digo por las palabras que la señora consejera dijo en comisión

viable de similares características que los planes de gestión que se les exige a otros consorcios espero que la señora consejera

con el resto de consorcios del país vasco digo esto porque en comisión como he dicho la señora consejera manifestó desde nuestro punto de vista un despropósito

hay que repercutirlas en el precio del agua a los habitantes e industrias de la zona la señora consejera desvía para costes

del entorno señora consejera señorías para esto no necesitamos ni esta cámara ni este parlamento para esto

llegan a un acuerdo y ya verán cómo lo hacen el gobierno tiene incumplimientos de treinta años incumplimientos incumplimientos con sus vecinos y con las industrias y actividades que se desarrollan en la zona incumplimientos con las directivas

de esta cámara por lo tanto señorías creo que no es lícito lo que se le está pidiendo al consorcio de aguas no lo entendemos no entendemos que el incumplimiento de un gobierno lo tengan que pagar los vecinos no lo entendemos por lo tanto

a que se pongan a trabajar de manera urgente y que den cumplimiento a esta iniciativa en caso de que se apruebe nada más muchas gracias eskerrik asko

estamos ante un tema que no por antiguo es menos sensible ya que estamos hablando

de las comparecencias habidas en la comisión de medio ambiente y política territorial el pasado día nueve de abril de la consejera señora oregi y de la presidenta del consorcio de aguas de busturialdea señora arriola

la directiva comunitaria marco del agua la ley vasca de aguas el plan hidrológico nosotros llegamos a las siguientes conclusiones en primer lugar creemos que no nos

que todos los grupos parlamentarios compartimos la necesidad de afrontar este problema buscando y tratando de encontrar una solución definitiva al mismo para nuestro grupo parlamentario

es una prioridad así lo dijo expresamente la señora consejera en la citada comparecencia

lehentasun handia bat dela gobernu honentzat esan zuen y todo ello teniendo como objetivo

consiste en proteger y mejorar la situación de todas las masas de agua reduciendo progresivamente la contaminación y suprimiendo gradualmente los vertidos realizados sin tratamiento previo

de la biosfera se ha hablado aquí de que treinta años que han pasado treinta años no se ha hecho nada o que se ha hecho poco sí que es cierto que se han hecho cosas que quedan pasos por hacer y en ese caso también habrá que hacer autocrítica todas las partes y ver

luze también hacer una puntualización a lo afirmado por la señora lópez de ocariz respecto a que el gobierno vasco que las aportaciones han sido a la administración del estado que han sido de las diputaciones según los datos que tengo

el gobierno vasco en convenios con la diputación cuarenta millónes noventa mil

algo más de sesenta y uno millónes simplemente puntualizar ese dato de que el gobierno vasco no ha aportado lo que tenía que aportar en esta materia creo que así se ha expresado así por otro lado

en el que se estableció una aportación máxima por parte del gobierno vasco de treinta y cinco millónes de euros para finalizar

según el plan de acción territorial de saneamiento redactado por el propio consorcio de aguas de busturialdea por tanto en esta materia también

en el sentido que el gobierno vasco no ha cumplido sus obligaciones el gobierno vasco ha cumplido

a rajatabla las obligaciones adquiridas en el convenio firmado en el dos mil tres con el consorcio de aguas de busturialdea

a la firma del convenio y al comienzo de las actuaciones se demostró que esas estimaciones presupuestarias realizadas por el consorcio de aguas de busturialdea no eran acertadas y que son necesarios aproximadamente otros cincuenta millónes de euros

por lo tanto entendemos que el convenio está agotado por parte del gobierno vasco y cumplido y que por tanto si se quiere continuar con la colaboración

procede firmar otro convenio que es de lo que se está tratando aquí también actualmente como se ha puesto de manifiesto

en la comparecencia no hay una consignación presupuestaria presupuesto del catorce porque

y un nuevo convenio entendemos que no puede ser una decisión unilateral y además tiene que cumplir una serie de requisitos tanto medioambientales como sanitarios y como económicos

por qué no hay convenio y aquí creemos que está la clave de todo este asunto por qué

el consorcio debe poner encima de la mesa un modelo de financiación un modelo de gestión viable y eficiente que garantice la pervivencia en el tiempo del sistema de saneamiento para el que se pide los cincuenta millónes para realización de las infraestructuras por tanto tan importante como finalizar las infraestructuras cómo se va a gestionar el servicio de modo adecuado no solo las infraestructuras actuales las ya realizadas

lamiaran así como todas aquellas que se pongan en marcha

además cumpliendo las directivas y leyes aplicables por lo tanto el problema

es fácil hay que reconocerlo sino la capacidad de gestionar las infraestructuras a posteriori cumpliendo la obligación de la directiva marco del agua de conseguir la suficiencia financiera para amortizar explotar y mantener las infraestructuras aportadas entendemos que la

a la financiación de las obras que faltan por concluir pero no a las suficiencia en la gestión es decir se solicita

sin una garantía de que se van a poder gestionar adecuadamente con posterioridad esas infraestructuras y qué pasará luego si una vez hecha esta inversión de casi doscientos treinta millónes nadie es capaz de gestionarlo el consorcio de aguas encargado de ello no es capaz de gestionarlo de quién será la responsabilidad

inicialmente presentamos unaenmienda a la totalidad en la que instábamos

a llegar a un acuerdo en el cual se pudiera materializar

se plantease un modelo de gestión viable y hemos llegado a una transaccional con el partido popular en el sentido de detallar más los términos del acuerdo

a que se pongan de acuerdo antes de finalizar el presente periodo de sesiones para suscribir

se recoja el calendario de las obras pendientes y necesarias las actuaciones y aspectos necesarios en la ejecución de las obras se presupueste la ejecución de esas obras en función de los plazos previstos

viable lo que decíamos no solo financiación sino financiación y suficiencia

agradecer al grupo popular el haber llegado a una enmienda transaccional a pesar de la comparecencia o la intervención crítica de la señora

lógicamente y animar al resto de grupos parlamentarios a sumarse a esta propuesta que creemos que es clara legal responsable y razonable no se está pidiendo

entendemos que es algo lógico que debemos buscar como administraciones responsables debemos buscar la garantía de que una vez puestas en explotación las obras se gestionen correctamente tanto por la salud de los ciudadanos evidentemente como también por la salud del medioambiente se trata en definitiva de un tema de sostenibilidad ambientar y económica algo tan evidente como cumplir la normativa

en todos los aspectos señor maeztu y exigir una gestión responsable besterik ez eskerrik asko eskerrik asko zorrilla jauna

conocidos los hechos de los que estamos hablando y leída la iniciativa original

transaccional que finalmente ha firmado el partido popular con el partido nacionalista vasco

nosotros votaríamos a favor de la transaccional firmada entre el partido nacionalista vasco y el partido popular en el caso de que se llegara a votar ante la iniciativa de eh bildu

sí gracias presidenta buenas tardes a todos en primer lugar saludar a quienes han venido a escuchar el debate

con muchos más argumentos de la postura para que esté más convencido a la hora de votar porque faltaba yo

en este primer turno no me voy a repetir en todo el valor que tiene la reserva de la biosfera en la obligatoriedad que debiéramos de imponernos todos en que la calidad de las aguas sea mucho mejor de lo que es porque como pudimos conocer a través de esa comparecencia que nos hizo el consorcio

es una vergüenza que se llame reserva de la biosfera de urdaibai a un agua que tiene la calidad que tiene que como todos sabemos es la calidad

aquí se ha hablado mucho de las competencias que tienen las diferentes instituciones es verdad que el gobierno central ha puesto mucho dinero un compromiso prácticamente cumplido la diputación foral de bizkaia no olvidemos gobernada por el partido nacionalista vasco se ha encargado de la adecuación de la red de saneamiento público de bermeo y gernika porque parece que el pnv aquí sí creía en esta iniciativa

realización de proyectos dirección de obra y el gobierno vasco que también hace una inversión económica es el encargado de las redes de conducción

podemos decir que la mayoría de las instituciones implicadas en este tema ha cumplido sus compromisos adquiridos inicialmente decimos la mayoría porque es verdad que el gobierno vasco

lo que tenía en sus competencias aunque lo queramos vender ahora de partidas económicas que parece que se hizo que no se hizo y que ahora se le quiere pasar la responsabilidad al consorcio de busturialdea por tanto

un único paso para darse por concluida una infraestructura a la que se le adjudicó una valoración económica sin hacer una planificación presupuestaria

sin ni siquiera hacer un estudio económico de lo que iba a costar y de aquellos barros estos lodos

la obra asciende a una cantidad presupuestaria mayor de la que se dijo inicialmente

pues todavía tenemos una cantidad de dinero superior a pagar y que parece que también queremos responsabilizar a los que hoy llevan la responsabilidad de dirigir el consorcio

se firma un convenio un convenio que hoy aquí se quiere obviar

comprometía tanto como realmente compromete si uno se lee todo lo que dice y sin embargo hoy el gobierno como dijo la señora oregi en su día reclama la búsqueda de sinergias y de consenso como si aquí eso no existiera cuando lo que se reclama es

porque aunque se ponga una partida presupuestaria ya de inicio en el presupuesto para el dos mil quince quizás lleguemos tarde a la solución del problema

que todos admitimos que debemos poner una solución sobre la mesa y casualmente se rompen todos los acuerdos en el año dos mil once porque aquí hay algo que no se ha dicho en aquella comparecencia que habló la señora oregi y que habló el consorcio de aguas de busturealdea

al consorcio de aguas del gran bilbao parece que la solución llegaba de una forma

qué pasa que en el dos mil once el pnv pierde las selecciones en los municipios en los que está implicado el consorcio de busturialdea y lo que en un momento parecía que estaba muy bien que gestionaran unos porque en los mismos los de un lado que los de otro

o es que no se controle sino que se paraliza la infraestructura y es donde estamos hoy pero es más

un parte de un artículo del señor rementeria que todavía era mucho más duro decía repetiré alto y claro le decía al señor lópez desconozco en qué afectaran las medidas adoptadas a cuestiones como las inversiones en el saneamiento de urdaibai

pero centrémonos en el saneamiento es la única zona de euskadi en la que el ejecutivo dispone de competencias expresas

ambientalmente más significativa de euskadi a todos nos corresponde garantizar y preservar ese equilibrio en especial al gobierno vasco

es responsabilidad del gobierno vasco debe ser que si gobierna el señor urkullu

que si nosotros no tenemos la mano dentro no queremos que se haga nada y esto es una vergüenza

entienden que todo tiene que estar dentro de la gestión que ustedes hacen y si ustedes no lo controlan

que tendría que tener otro nombre y da igual que los ciudadanos que allí están que no les importa los que les votan a ustedes que son unos cuantos

y que al final acabe petando la infraestructura por el mero hecho de que los señores del consorcio se agarran sobre unos estatutos

y qué quieren que les diga no soy yo la mayor defensora de bildu pero es que me parece una tomadura de pelo y es lo que está pasando con el consorcio de busturialdea otra cosa es que digamos

defendemos el hecho de que las estructuras administrativas haya que ir a menos tengamos que ahorrar en dineros intentemos que todo sea

quizás el consorcio de busturialdea sea uno de esos que pueden acabar formando parte de ese consorcio del gran bilbao pero no porque les convenga a los señores del pnv

el problema adquiere pues bueno las tonalidades que tiene porque como digo es que

como gran alcalde de mundaka y debe ser que a día de hoy

da igual el dinero del pnv porque lo empezó ibarretxe da igual todo

o entre comillas que se joroben los que viven por allí ya llegaremos nosotros en otra ocasión

nacionalista vasco y me parece pues como digo una tomadura de pelo por otro lado diré señora lópez de ocariz que creía que usted se había arrepentido del acuerdo

crítica con la gestión que ha llevado el partido nacionalista vasco que me parece muy bien que estoy de acuerdo pero

porque aquí habla de firmar un nuevo convenio esto ralentiza la ejecución de la obra habla de un calendario que contemple las obras pendientes todos sabemos cuál es la obra pendiente lo reconoció hasta la consejera

habla de que se presupueste las cantidades necesarias para esto no hace falta hacer un convenio

de la comunidad autónoma en la mesa por lo tanto creo que esta obra necesita de una solución ya necesita que seamos capaces

y que seamos capaces de hacer políticas garantistas que da igual quien gobierne que los servicios de los ciudadanos estén cubiertos y que no intentemos tener control de todo porque sino

no puede usted salir aquí y mentir y no me lo puede hacer a la cara

usted miente cuando dice que es prioritario el saneamiento de urdaibai para el pnv mentira

en lo que llevan gobernando yo sé que es prioritario el tren de alta velocidad trescientos sesenta y seis millónes cada año presupuestario lo sé no me queda ninguna duda con dos kilómetros del tav pagamos el saneamiento de urdaibai no es prioritario para ustedes

segunda mentira usted sabe muy bien que desde el año dos mil cuatro dos mil cinco se sabe perfectamente que el gobierno vasco para cumplir su parte

tiene que poner cerca de cincuenta millónes antes eran menos pero van pasando los años y los costes van subiendo

a seguir subiendo y lo sabe perfectamente y lo sabe tan bien que aquellos

sin estar redactados los proyectos podía haber puesto

una vez que se sabe es cuando hay que poner ese dinero y ustedes no lo están poniendo

argumentar en este debate es la del modelo de gestión por qué no es capaz

sus infraestructuras por qué se pone en cuestión

gestor y un equipo técnico que se encontró una deuda de tres millónes de euros que han tenido que depurar nunca mejor dicho de tres millónes de euros

han seguido haciendo inversiones y además han hecho están consiguiendo una gestión directa de los recursos humanos dando sentido a la palabra servicio público por qué tienen que demostrar que saben gestionar o que pueden gestionar

que ahora no van a saber gestionar de qué jeta eso es mucha jeta porque la verdadera razón

la verdadera razón la dijo en su día el señor aburto

cuando firmó el acuerdo para ampliar y para dar trescientos sesenta y seis millónes de euros al consorcio de aguas de bilbao

en eso no hay ningún problema de gestión ahí no hay ningún problema lo gestionan ustedes

esta ampliación corrobora la apuesta de la diputación foral de bizkaia por el consorcio de aguas bilbao bizkaia

por un único consorcio de carácter territorial que desde los principios de equidad y solidaridad

un servicio homogéneo que es lo que ustedes quieren para todos sus municipios con independencia de su realidad geográfica y demográfica así como una gestión integral eficiente

única y uniforme eso es lo que ustedes nos quieren un monopolio en la gestión del agua en bizkaia le sobra a ustedes el consorcio de busturialdea

que se puede hacer una gestión mucho más eficaz y eficiente y la hace bildu sí mucho más eficaz y eficiente y lo puede hacer y ustedes quieren subir las tarifas

el consorcio de busturialdea es un problema y quieren cargárselo lo que ustedes verdaderamente les revienta en toda esta historia es primero perder elecciones cómo pueden castigar a los ciudadanos con los grandes gestores que son ustedes y segundo que entre bildu a gestionar y lo haga de una manera más eficaz y mucho más eficiente eso es

excusas baratas estamos en el año dos mil catorce es prioritario para todos

las aguas fecales las aguas residuales se siguen vertiendo directamente a la ría

que está funcionando al cuarenta por ciento de su capacidad después de destinar ingentes cantidades de dinero público y en urdaibai en gernika en este caso hay una edar que está apunto de entrar en colapso

incumplimiento el gobierno vasco de su responsabilidad incumplimiento de las directivas europeas hoy dos mil catorce sean los ciudadanos los habitantes de urdaibai las actividades económicas las que tengan que hacerse de los costes de esas infraestructuras porque en este periodo hay otra directiva europea que dice que los costes hay que repercutirlos en el precio del agua eso no se puede hacer eso es una auténtica irresponsabilidad

primero el modelo de gestión sin haber hecho las obras cómo se va a hacer un modelo de gestión

habrá que hacer las obras y luego saber qué infraestructuras tengo y saber con eso

mire de verdad solo son meras disculpas para no cumplir con la obligación para no poner un euro en los presupuestos porque ya lo ha anunciado el gobiern

de qué estamos hablando de qué el gobierno va a seguir incumpliendo

y esto es así han optado por no hacer frente a las necesidades de la reserva de la biosfera

bandera que en ocasiones la sacamos y la ondeamos y en este momento la tienen enterrada

esa es la trayectoria en estos treinta años por lo tanto creo que tiene que ser una apuesta de gobierno

si realmente este gobierno quiere cumplir con sus responsabilidades y atender una necesidad urgente

el consorcio que creo que ha hecho una labor importante en estos últimos años

las cuentas del propio consorcio tal y como lo explicaron en esta cámara por lo tanto déjense ciertas

a gobernar y gobernar en este caso es ejecutar

y para hacer un plan de gestión tiene que haber algo que gestionar

pues para eso es para lo que se tienen que poner a trabajar mejor hoy que mañana y eso es lo que pedimos señora rojo en nuestra iniciativa y señora rojo

se aprobó una iniciativa de toda la cámara en la que se instaba al gobierno del señor lópez presente un solo resultado del dos mil diez al dos mil doce

del consorcio de aguas de busturialdea que han venido a presenciar este pleno

respecto a lo manifestado por la señora rojo hemos de decir que nos sorprende

bastante llamativa no la postura del grupo socialista y ello principalmente por dos motivos y es que uno no daba crédito a lo escuchado

cuando el partido socialista estuvo tres años y medio en el gobierno y no destino ni un solo euro

el pp también en su coalición con el partido socialista creo que no influyó lo suficiente en el partido socialista para que consignasen alguna partido a este respecto digo la defensa y los

andando y también me sorprende o nos sorprende porque en una carta de agosto del dos mil doce del entonces director de ura señor

a la presidenta del consorcio de aguas de busturialdea de la que creo que tiene conocimiento porque en una respuesta parlamentaria de fecha veintiséis de mayo de dos mil catorce se le hacía referencia a esa carta de agosto del dos mil diez

el director de ura del gobierno socialista lo mismo que se está diciendo ahora le dice sin embargo esta financiación está condicionada a que el consorcio de busturialdea explique por escrito de forma satisfactoria de qué manera

existentes y las que están en fase de construcción ponía luego el detalle de lo que tenía que explicar

a las entidades locales y que resumidamente son las indicadas en los puntos anteriores es decir

del gobierno socialista ante el consorcio de aguas de busturialdea era exactamente el mismo que está planteando ahora el gobierno del partido nacionalista vasco y esto también sirve para el señor maeztu que decía antes que los criterios son los mismos no han cambiado

igual que son legales los que hacía referencia al medio ambiente y habrá que hacer esfuerzos para cumplirlos

toda y en todos los aspectos yo no creo que haya llamado mentiroso

administraciones estatal autonómica foral también con una pequeña aportación del consorcio en los últimos veinticinco años

de euros en infraestructuras hidráulicas incluso antes de que se materializara la transferencia en materia de aguas a la comunidad autónoma del país vasco hace ahora más de veinte años

inversiones en esta materia sí ríanse ríanse como ven pasos se ha dado y quedan por dar es evidente que quedan por dar pero yo me pregunto dónde estaba

durante estos últimos veinticinco años ahora muy fácil subirse al carro

más papistas que el papa pero antes dónde estaban la cantinela del tav está muy bien ya la conocemos pero

pero también no de cualquier manera le iba a hacer una relación de estas infraestructuras hidráulicas pero no se las voy a hacer porque están en la comparecencia de la presidenta del consorcio ha sido prioritario para ustedes este tema yo soy nuevo en esta legislatura pero usted señor maeztu creo que es veterano

en esta cámara más legislaturas cuántas propuestas ha presentado el señor maeztu la pasada legislatura para que se incluyese en los presupuesto de esta comunidad autónoma una partida para el saneamiento para finalizar las obras del saneamiento de urdaibai

por qué dudamos de la gestión por qué no es capaz nadie ha dicho que no sea capaz nadie ha dicho que no sea capaz lo que se ha dicho es que se ponga un plan un plan de gestión que visualice la viabilidad técnica y económica que lo pongan encima de la mesa y a partir de ahí hablamos a partir de ahí hablamos hay datos indicios que pueden indicar cosas

lo que está pasando en el consorcio lo que ha pasado con bajadas subidas

aludido en este pleno en el cual se habla de desequilibrios en las operaciones corrientes por actuaciones del consorcio yo no voy a mencionar eso

isiltasuna mesedez bestela kalera dicen que quieren subir las tarifas quieren subir las tarifas les diré que a día de hoy la tarifa de agua impuesta

es un treinta y cinco por ciento más cara para las viviendas y un ciento veintiséis por ciento más cara para la agricultura y la industria que cuando el consorcio de aguas de busturialdea era gestionado por el partido nacionalista vasco si eso es una buena gestión que venga dios y lo vea y además de todo eso

de ser más cara lo que hacen es que la inversión ejecutada por el consorcio en el año pasado el año dos mil trece ha sido escasamente del quince por ciento de lo aprobado y con esos recursos parece que se cubren otras necesidades eso nos da pie a pensar nos puede

como las que usted hace de que puede haber problemas para realizar las inversiones mínimas

y esto sin contar que en breve tendrán que hacerse cargo del coste de la gestión de la nueva depuradora de lamiaran y del coste eléctrico del sistema de bombeo del nuevo sistema de saneamiento por tanto

sí por supuesto que sí y lo ha sido y ahí lo demuestra en las inversiones que se han realizado pero que sea viable económicamente la gestión

sí gracias presidenta y buenas tardes otra vez mire señor zorrilla es que yo creo que ustedes creen que venimos aquí o nos ven igual jóvenes porque yo soy de las más jóvenes de la cámara y se creen que nos chupamos el dedo

y hombre una ya lleva tiempo en esta cámara y en política como para preparase un poquito los temas antes de llegar

ustedes fueron los que dejaron un pufo de tres millónes de euros al consorcio cuando dejaron la dirección del consorcio el consorcio actual estuvo dos años

el tribunal vasco de cuentas hizo el informe de la gestión del partido nacionalista vasco en el año dos mil once por tanto el causante del desequilibrio económico es el partido nacionalista vasco que es quien lideraba el consorcio de busturialdea hasta que perdieron las elecciones

es una tomadura de pelo todo lo que ustedes hacen porque mientes creyendo que los demás

voy a continuar con el señor rementeria que espero que no le moleste y no me acuse de plagio dice comparto el cien por ciento hago mías sus palabras me alegra sin embargo que este gobierno diga ahora públicamente que apuesta por el saneamiento de urdaibai

y el sonrojo producido por tanto comentario en la dejadez de sus funciones continúa diciendo

espero que los presupuestos yo digo del dos mil quince él decía los socialistas

y no quede al igual que nos tienen acostumbrados en meras soflamas y titulares de prensa firmado unai rementeria es que puede firmar natalia rojo o miren gallastegui ustedes se creen que aquí nos chupamos el dedo el partido socialista

no puso partidas presupuestarias porque había una deuda que tenía el consorcio que no podían ejecutar nada de lo que tenían hasta que no estuvieran

motivo por el cual se informó que el partido socialista no metía dinero y ustedes por cierto nunca pidieron que se pusiera nada entonces no nos vengan aquí ahora de salvadores de la patria y de la reserva de urdaibai porque a ustedes les da igual si no están ustedes mandando

tienen un problema y han de mirárselo sobre todo da entender que en euskadi

y no pasa nada no pasa nada ha gobernado el partido socialista y no se ha caído el país fíjese llega bildu al consorcio y limpia las cuentas tres millónes de deuda

y no venir aquí a leernos datos porque cogemos la hemeroteca y en función de quién la lea y qué coja pues hombre cogemos un corta y pega no leemos todo el párrafo

en fin no me haga hablar de las cosas que dice hoy en día el director de ura también de estas cosas porque tendríamos mucho que decir pero hoy no le toca a él hoy lo que toca es

tenemos un problema que aquí todos somos capaces de decir que hay que solucionar tenemos un agua que es de vergüenza

la única reserva que tiene la comunidad autónoma y ustedes dicen

segundo que estos son malos gestores cuando ustedes dejaron el pufo hombre mire por favor

pues hombre un poquito paradójico sí que es pero es que ustedes eso sí

ahí no importa con quién pactamos ustedes lo que no tienen es principios es lo que les pasa

si dejamos de gestionar les jorobamos a los de bildu oiga mire este país no es suyo o

y empiezan a reconocer que alguien puede gestionar bien aunque no forme parte del partido nacionalista vasco o así nos va este país

unos problemas para hablar de debates políticos que no terminamos de avanzar porque si todos reconocemos que esta es una prioridad lo dice usted que es el partido que sostiene el gobierno lo dice el partido popular que es quien ha firmado con ustedes la enmienda

digo o que lo van a poner a bote los del pueblo hombre las cosas se pagan y esto tiene un problema de aguas

que no sé si están esperando a ver si recuperan algún municipio para ver si rascan el poder del consorcio

en fin tres millónes de euros de deuda eskerrik asko rojo andrea eztabaida amaituta bototara jarriko dugu